en definitiva con su propuesta paga más el que trabaja que el que vive de las rentas beraz

así sí se logra que las empresas paguen los impuestos que les corresponden por sus beneficios y no con los tan publicados tipos mínimos del partido nacionalista y del partido socialista que no son tales

sin límite que no controla nadie y que beneficia otra vez

también esperamos que nuestras propuestas de resolución sean aprobadas y apoyadas no solamente por el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi sino incluso también por el resto de grupos

cincuenta propuestas de resolución la mayoría de ellas ya defendidas no todas pero la mayoría de ellas ya defendidas en otros debates semejantes y que vienen a recoger las principales propuestas de upyd en relación a la fiscalidad en euskadi muchas de ellas ya sobradamente conocidas por todos ustedes no me voy a parar demasiadoen cada una de ellas

repaso general a lo que estas propuestas de resolución defienden y proponen hay efectivamente un grupo de propuestas de resolución que vienen a pedir la modificación del entramado institucional la modificación del modelo foral

de las competencias fiscales de las juntas generales de los territorios históricos al parlamento vasco con el objetivo de defender una sola política fiscal por lo tanto la igualdad

hay una propuesta de resolución en concreto la número cinco que dice expresamente que este parlamento se comprometerá se compromete a impulsar una reforma fiscal porque nosotros como venimos defendiendo durante los últimos años sí pensamos que es indispensable impulsar

no una reforma fiscal cualquiera pero sí una reforma fiscal para el conjunto de euskadi que tenga como objetivo lograr una fiscalidad más justa

que suponga una distribución más justa de las cargas y que sirva para sustentar

y el impulso a la actividad económica y a la generación de empleo estable y de calidad

para todos los ciudadanos hay un grupo de propuestas de resolución que hacen especial incidencia en lo que es la lucha contra el fraude fiscal la mayoría de ellas son también perfectamente conocidas por todos ustedes porque muchas de ellas han sido ya defendidas e incluso algunas de estas medidas están incluso incorporadas en el pacto fiscal suscrito entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi incluye como no podía ser de otra manera

contra el fraude fiscal el incremento del número de inspectores y del número de inspecciones fiscales la formación continúa de los inspectores y de los subinspectores

y el reforzamiento y agilización de los mecanismos de colaboración coordinación transparencia intercambio de información entre todas las administraciones tributarias diputaciones forales agencia estatal de administración tributaria y comunidad foral de navarra

gipuzkoa y álava que estaría recogido en este plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal proponemos también como hemos defendido desde hace cuatro años

que facilitan el fraude el engaño o la fuga de ingresos fiscales como son las sociedades de promoción de empresas insisto ya he defendido esto en varias ocasiones años atrás proponemos también el aumento de las sanciones tributarias y de los plazos de prescripción

y sitúen el fraude como comportamiento inadmisible que atenta contra la igualdad de los ciudadanos lo cual por cierto y ahí está señalado deberá ir debe ir acompañado de un compromiso claro y visible de las administraciones públicas contra el fraude es decir no parece razonable que se exija a los ciudadanos que

cuando los ciudadanos en muchísimas ocasiones observan que las administraciones públicas

para luchar más y mejor contra el fraude fiscal proponemos también la elaboración anual y presentación en sede parlamentaria de estudios sobre el fraude fiscal

para explicar la evolución del plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal que efectivamente parece ser que en próximos

ponerse en marcha para que exponga

los resultados obtenidos de modo que a la vista de estos resultados

mejorado también incluimos como no podría ser de otra manera y como en otras ocasiones lo hemos planteado crítica radical a cualquier tipo de medida

incluida la última amnistía fiscal impulsada por el gobierno de españa proponemos instar a las diputaciones forales a aplicar estrictamente su normativa

generados en un periodo superior a dos años y que se obtenga de forma periódica o recurrente evitando interpretaciones ventajosas de dicha normativa para determinados deportistas profesionales y proponemos que se revisen la actual tributación de las rentas de capital

a la equiparación con el tratamiento de las rentas del trabajo y a la eliminación de los sistemas duales proponemos analizar y corregir en su caso

aquellas deducciones lineales que no tienen en cuenta las diferencias de ingresos de los contribuyentes proponemos al menos analizar y corregir en su caso aquellas deducciones que no tengan en cuenta las diferencias de ingresos

proponemos analizar y limitar la deducción por gastos personales en el impuesto de sociedades e introducir progresividad en las deducciones por adquisición y alquiler de vivienda proponemos en relación también con la última amnistía fiscal impulsada por el gobierno de españa proponemos que este parlamento

a que remita a la fiscalía la información que tenga sobre capitales de posible origen ilícito

a toda la documentación es decir que colabore con la justicia remitiendo la información sobre esos capitales al ministerio fiscal de acuerdo con lo dispuesto en la ley general

pedimos también al gobierno en este caso al gobierno de españa a que dé todos los pasos que sean necesarios para acabar con los beneficios fiscales de los que disfruta la iglesia católica

un impuesto sobre sociedades armonizado en euskadi y armonizado con el resto del estado y defendemos también la armonización del impuesto

elevándolo a cinco años con el fin de facilitar la lucha contra el fraude e igualarlo con el plazo vigente a efectos penales proponemos también y defendemos el agravamiento del delito fiscal aunque no sea de nuestra competencia proponemos

en esta ocasión en una de las propuestas de resolución la exigencia para que se supriman las injerencias políticas en la finalización de las actuaciones inspectoras

a implementar medidas urgentes para erradicarlas insisto como decía hoy por la mañana hay determinadas actuaciones inspectoras que son paralizadas por orden del de arriba digamos normalmente cargo político

y sigue ocurriendo a día de hoy y proponemos también suprimir

y oscurantismo proponemos que este parlamento diga que defiende que asuman una responsabilidad solidaria en el pago de la deuda tributaria aquellas asesorías fiscales que planifiquen diseños de ingeniería fiscal y que tengan como fin primordial el ahorro

y la elusión fiscal proponemos la supresión del límite de duración de las actuaciones inspectoras una vez iniciadas

desincentivando así el comportamiento de determinados contribuyentes incumplidores sometidos a inspección por no aportar documentación o hacerlo incompleta proponemos también el establecimiento de un recargo del tres por ciento sobre el tipo de gravamen del impuesto sobre sociedades aplicable a las entidades financieras

a las exigencias de equidad y solidaridad en estos momentos de crisis económica y proponemos entre otras y en relación al impuesto sobre sociedades y en el ámbito

y la deducción por reinversión estas son algunas de las propuestas de resolución que nosotros hemos planteado y que esperamos puedan contar

algunos de los grupos si efectivamente consideran que están de acuerdo

se recogen en relación al resto de propuestas de resolución del resto de grupos votaremos en contra de la mayoría de las propuestas de resolución planteadas por el grupo eh bildu aunque en alguna ocasión

y votaremos en contra de todas las propuestas de resolución planteadas por el grupo popular es decir de las dos propuestas de resolución planteadas por el grupo popular y en relación a las propuestas de resolución planteadas por el partido nacionalista vasco y partido socialista de euskadi efectivamente no tenemos ningún inconveniente en votar a favor de algunas de ellas

y por lo tanto como ya he dicho antes en este pacto fiscal que ustedes han firmado consideramos que hay

desde luego son insuficientes muchas de ellas en relación sobre todo a la lucha contra el fraude pero votaremos a favor de todas aquellas que consideremos pues pasos positivos para lograr un sistema fiscal más justo más progresivo y también de aquellas medidas que ustedes han acordado para luchar más y mejor contra el fraude fiscal

de la número dos de la número tres de la número cuatro votaríamos a favor también de la número seis

a favor de la número siete a favor de la número ocho

a favor de la número diez en relación a la propuesta de resolución número once en relación al tratamiento de la vivienda habitual nosotros sí pensamos que esta deducción por vivienda habitual

pero tampoco del modo en que ustedes lo plantean pensamos que habría que introducir una mayor progresividad de tal forma que haya mayores deducciones para aquellos ciudadanos con menor nivel de renta votaríamos a favor de la propuesta de resolución número doce también de la trece

en concreto la no compensación de rendimientos negativos con otros tipos de renta en la regulación de los rendimientos de actividades económicas no compartimos esto y no entendemos realmente

tampoco votaremos a favor porque pensamos que aquí hay margen debería haber margen

progresividad a favor de la propuesta de resolución número dieciséis a favor de la propuesta de resolución número veintiuno a favor de la propuesta de resolución

veinticinco y de la veintiséis no porque no estamos de acuerdo no llega tan lejos como nosotros nos gustaría en relación

de comercio pensamos que no basta con la limitación de los beneficios fiscales en relación al fondo de comercio sino que habría que suprimir la posibilidad de su amortización

la mayoría de las que no he citado votaríamos en contra o nos abstendríamos y en relación a la propuesta

o quien corresponda se explique exactamente a qué tipo de tasas se refieren para que nosotros pudiéramos votar a favor en contra o abstenernos

estas son nuestras cincuenta propuestas de resolución no tenemos ningún problema insisto aunque el pacto fiscal firmado entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi

y desde luego mantiene el modelo foral no tenemos ningún problema en votar a favor de todas aquellas iniciativas que nosotros consideramos puedan servir para

más justo y más progresivo y a favor de también aquellas medidas que sirvan para luchar más y mejor contra el fraude no todas las que deberían plantearse están planteadas en su acuerdo ustedes lo saben bien pero en todo caso si nosotros consideramos que pueden ser un paso no tenemos ningún problema

hiru osoko bilkura gai honi buruz nos decía la señora gorospe el pasado quince de febrero hace apenas siete meses

lo siguiente hace casi nueve meses mantuvimos esta misma discusión

en quince meses pero nos decía más nos decía que creemos que este debate tiene un objetivo mediático eso nos decía entonces usted

preguntarle señora gorospe si este pleno de política fiscal como le decía el segundo en siete meses y el tercero en quince meses sigue teniendo un objetivo mediático como usted señalaba entonces para el partido nacionalista vasco balance por tanto dos plenos de política fiscal en siete meses y tres en quince meses creo que es la primera vez que en una legislatura en menos de un año hay dos y se celebran dos plenos de política fiscal ondorioa

foru aldundian algunos seguimos siendo coherentes y hemos hecho los deberes y aquella propuesta fiscal que planteamos e hicimos pública al conjunto de la ciudadanía vasca la hemos presentado

foral de álava y otros entre la flexibilidad y el movimiento están en lo que están en traernos aquí hoy una nueva escenificación suscribo las palabras de entonces sus palabras señora gorospe que ese pleno

pero hoy añadiría más hemos asistido a un paripé porque satisface las urgencias de unos claro señor lehendakari los presupuestos apremian

sino más allá del país vasco por eso están hoy ustedes aquí y por eso hoy celebramos el tercer pleno de política fiscal en quince meses o el segundo en siete meses pero si me permiten además de mediático paripé

si el modelo fiscal que hoy plantean ustedes que es el de bildu y lo ha dicho aquí muy bien el señor pastor en varias ocasiones textualmente es el que hemos hecho en gipuzkoa

es tan bueno para reactivar la economía y para obtener recursos

antes a las tres juntas generales cuando precisamente

por qué ahora volvemos a lo de las urgencias que como son las de algunos solo ellos entienden

por qué ahora cuando no va a tener efectos esta reforma hasta el dos mil quince dentro de dos años justo en el momento ya cuando estamos saliendo de la crisis

esos indicadores que empiezan a cambiar pero claro no será gracias a la actividad de este gobierno del lehendakari sin presupuestos con solo dos proyectos de ley presentados en esta legislatura será gracias a aquellos que realmente

aquellos que se encontraron una situación y una herencia desastrosa como es el gobierno del partido popular gracias a esas reformas

absolutamente necesarias que ya hace tiempo se hicieron en otros países de la unión europea y que hoy tienen los indicadores que tienen aquí se está empezando a dar la vuelta a la situación

a algunos vuelvo a repetir por qué lo han demorado tanto por qué no antes por la convergencia de los intereses de dos fuerzas políticas

antes de la presentación de los presupuestos del ejercicio siguiente septiembre octubre la presentación de los nuevos presupuestos

hace unos meses cuando hubiera sido más efectivo para ese tejido empresarial que había que reactivar y aquellas familias que había que apoyar

por qué no entonces el partido socialista presentó esta propuesta en las tres juntas generales por qué no lo hicieron señorías por qué no señores nacionalistas el acuerdo

con ustedes entre el partido popular y el partido nacionalista vasco

con líneas rojas muy claras que luego se han convertido en pelos que se han dejado en la gatera por qué conversaciones entre el partido popular y el partido nacionalista vasco que estaban muy avanzadas y como digo que tenían líneas rojas muy marcadas para buscar de la noche a la mañana otro compañero de viaje

de esa exclusividad que parece que se ha pedido en ese acuerdo otro nuevo paripé se habla de un acuerdo abierto cuando todo el mundo

sabe que ese acuerdo está cerrado entre dos fuerzas políticas quizás porque alguien en ese acuerdo

una cierta exclusividad quizás necesitaba figurar porque no figura en otros lugares ya que se ha quedado residualmente en el país vasco con apenas ocho ayuntamientos por qué señores socialistas

ahora esa fijación por la armonización

se desarmonizaron respecto a álava y bizkaia y por qué

qué casualidad otra casualidad que aparece ahora por qué ahora se han enredado y se han obsesionado con el tema de armonización que yo más bien diría para algunos

y no nos plantean también como ha dicho nuestro portavoz esta mañana la armonización de paso con el resto de españa

la solución armonizadora señores socialistas como la respuesta a todos los males que nos acechan

si llegado el caso si algunos se siguen dejando pelos

arreglo ha repetido la señora gorospe en varias ocasiones

milímetro este acuerdo del ámbito competencial que tenemos señora gorospe esta afirmación si cabe

voy a entrar ya en el acuerdo porque necesitaba hacer yo creo que es bueno poner de manifiesto lo que todos los ciudadanos vascos ya conocen que

y al hilo de lo que decía la presidenta hemos hecho una referencia muy concreta

a las competencias de las instituciones de los territorios históricos juntas generales y diputaciones forales y bueno esa va a ser la realidad que quizás eso es lo que les está produciendo señores

de cabeza que ahí es donde su pacto parece que hace aguas claro que es posible la abstención de bildu

sí me gustaría centrarme en el acuerdo y en nuestras propuestas de resolución señores desde luego no apoyamos el acuerdo fiscal

se concreta demasiado ya lo sabíamos porque desde luego sabemos que no es el acuerdo que necesita la ciudadanía vasca

el modelo del partido popular nuestro modelo el modelo del partido popular

es el modelo de la reactivación de la economía y la creación de empleo sí señor pastor

y el que vamos a empezar a impulsar

es el modelo que apoya a las familias numerosas a los desempleados ayudas a la contratación a los emprendedores a los autónomos

este modelo así lo reconocemos y lo contemplamos en la propuesta de resolución presentada porque de dónde va a salir la recaudación de su propuesta

del ciudadano de a pie esa recaudación que ya algunos estudios dicen que es marginal al ciudadano que alquila una vivienda al ciudadano que compra

a ese pequeño ahorrador que desgrava en su plan de pensiones

son los ciudadanos de a pie lo que queda patente con su reforma y con su acuerdo señorías señores del partido nacionalista vasco y del partido socialista es que

no va dirigida a que paguen más los que más tienen porque aquí van a pagar

los ciudadanos de a pie las clases medias la mayoría de los ciudadanos vascos los pequeños ahorradores las familias los desempleados

esos son los que van a sufrir los efectos de su reforma fiscal que por cierto

y a que paguen más los que más tienen como ustedes dicen

va dirigida a esos alaveses que ganan treinta y cinco mil euros al año que es de donde se va a producir el cuarenta y dos por ciento de la recaudación

fiscal desde luego no es nuestro modelo vuelvo a repetir nuestro modelo fiscal es el que se dirige a las familias a las empresas a los autónomos

destinado a las familias a reactivar nuestra economía nuestro tejido empresarial y porque creemos en ello lo practicamos y allá donde gobernamos

foral correspondiente veremos qué hacen ustedes y cómo se retratan ustedes ante esta iniciativa presentada por el partido popular de apoyo a las familias

de nuestro país y señor pastor por eso es importante decir la verdad a los ciudadanos a esa

de su reforma fiscal efectivamente señorías en su propuesta en la propuesta que han acordado ustedes la del partido socialista ya sabemos que era porque era la misma

con bildu la que también no le parecía muy bien al señor bilbao por aquel entonces ahora parece también que es la del partido nacionalista vasco es la suya y nosotros la respetamos pero desde luego me

que nada tiene que ver con aquella propuesta que ustedes y nosotros estábamos discutiendo en el mes de julio y propuesta de paso que hoy aquí en este pleno no se han atrevido a plasmar en su integridad

de la ciudadanía vasca y acabando señora presidenta la propuesta de resolución a la que he hecho ya referencia

creo que es muy clara hace referencia a que dentro del órgano de coordinación tributaria

para incentivar la actividad económica generar empleo ayudar a las familias a los pequeños ahorradores a los autónomos a los profesionales

y medianas empresas y para ello nuestro modelo es radicalmente distinto al suyo porque nuestro modelo va dirigido a reducir la presión fiscal a todos estos sectores y su modelo el modelo del partido nacionalista vasco y del partido socialista va dirigido a incrementar la presión fiscal a estos sectores

exigimos al gobierno y al conjunto de instituciones y nos parece muy oportuna esta mención que se respeten las competencias que recogen nuestro marco jurídico

y la ley del concierto económico y desde luego hacemos un llamamiento a la lealtad institucional y al respeto institucional respecto a las propuestas planteadas

pues están en el otro extremo poca concreción en las propuestas presentadas en forma conjunta del partido nacionalista vasco y del partido socialista

va a votar en contra de la nuestra que se ciñe al marco

a las familias a los ahorradores y a las pequeñas y medianas empresas para reactivar la economía fomentar y crear empleo y mantenerlo y desde luego usted

presidenta señorías voy a presentar

a esta cámara en diez bloques que conforman las bases del acuerdo que hemos suscrito entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista

es dar continuidad a la política que se ha iniciado en ese acuerdo para conseguir una euskadi más moderna solidaria sostenible y competitiva y en el acuerdo suscrito como ya ustedes conocen porque así además ha sido presentado

esta cámara hay concreciones hay objetivos pero sin embargo en las resoluciones hay propuestas

a las bases y a los principios que rigen esos objetivos y esas concreciones se hace así porque se pretende que este camino que se inicia hoy sea un camino que tenga su continuidad en las juntas generales de los tres territorios históricos

lo que hacemos hoy es poner en pista una reforma fiscal que queremos que se haga donde está la competencia normativa buscando la concreción en ese espacio político e institucional a partir como digo

que se ha suscitado con el acuerdo político del partido nacionalista vasco y del partido socialista y con el debate fiscal que estamos teniendo hoy aquí

de esas treinta y dos resoluciones que los socialistas conjuntamente presentamos con el partido nacionalista vasco

a los principios generales de esta reforma fiscal y ahí se presentan cuatro resoluciones donde se pretende que la fiscalidad sea esa herramienta que logre la mayor igualdad solidaridad y justicia

por la que hemos trabajado siempre los socialistas buscando una sociedad más justa en la que ningún ciudadano o ciudadana se quede abandonada a su suerte hay una segunda resolución que se refiere a una nueva orientación de la política fiscal

que garantice un óptimo equilibrio entre ingresos y gastos públicos y que establezca medidas más eficaces de lucha contra el fraude y que también impulse la actividad económica generadora de empleo una tercera resolución se refiere

trabajen esta reforma fiscal en el seno del órgano de coordinación tributaria hay una cuarta

dentro de ese primer bloque donde se hace la configuración de un sistema tributario de equidad progresividad solidaridad suficiencia y eficiencia donde se fortalezca la competitividad de nuestro tejido productivo compuesto fundamentalmente por pequeñas y medianas empresas

de riqueza y la creación de empleo también se plantea en esa cuarta resolución la reducción y eliminación del fraude fiscal la colaboración con la administración de justicia

el minimizar las posibilidades de elusión fiscal el asegurar la tributación de los distintos contribuyentes conforme a su verdadera capacidad económica y a incentivar la sostenibilidad y mantenimiento del medio ambiente en el segundo bloque de resoluciones

una amplia resolución está referida a la armonización colaboración y coordinación fiscal que

también de este parlamento y de la que se ha hablado suficientemente esta mañana por lo cual

muchas consideraciones al respecto en cualquier caso en función de esa resolución el gobierno vasco elaborará en el plazo de cuatro meses las propuestas normativas que sean precisas

de treinta de mayo de armonización colaboración y coordinación fiscal en relación con aquellos elementos sustanciales que se hayan identificado como no armonizados por parte del órgano de coordinación tributaria trasladándolas

a los efectos oportunos hay un tercer bloque en el que también hay una resolución y es una propuesta relativa a las actuaciones contra el fraude fiscal en este sentido esa creación que ya algún portavoz de otro grupo la ha señalado amablemente como muy positiva perseguida incluso

upyd efectivamente se pretende constituir esa creación de la comisión de lucha contra el fraude fiscal y también se plantea la interconexión de las bases para los datos tributarios para que sea más difícil escaparse

responsabilidades y obligaciones que cada contribuyente tiene con su hacienda

a actuaciones contra la elusión fiscal y ahí hay una resolución con varias líneas de trabajo se pretende que haya medidas que refuercen

se pretende revisar permanentemente la eficacia del régimen sancionador tributario y en particular para las infracciones relativas a la falta

y a la resistencia obstrucción o negativa a las actuaciones de la administración tributaria hay un quinto bloque con nueve resoluciones y ahí ya entramos en las figuras impositivas

y ahí se plantean también como he dicho antes generalidades que se concretarán porque están ya concretadas en el acuerdo con el partido nacionalista vasco en el trámite de las respectivas juntas generales

hay una referida al irpf y a la generación de nuevos tramos tres nuevos tramos

a la progresividad en la tributación de las rentas de capital hay otra en relación al tratamiento de las rentas irregulares para conseguir una mayor equidad simplificando y estableciendo un límite para interacción reducida hay una

anual en el tratamiento a la vivienda hay otra relacionada al tratamiento de las deducciones por aportaciones a planes de previsión social complementarios

de actividades en régimen de módulos de estimación de ingresos estableciendo un nuevo régimen de estimación directa simplificado para el conjunto del sector primario hay una propuesta en relación a la limitación de determinados gastos

etcétera hay otra referida a revisar el tratamiento de la deducción por edad otra a revisar a la baja el tratamiento de la deducción por donativos

de las figuras impositivas en relación a rentas hay también un bloque que es el sexto con diez resoluciones de propuestas relativas al impuesto sobre sociedades y en esta la primera es una que no debía de encontrar la señora pinedo que es que el impuesto sobre sociedades tenga un mínimo tributario me alegro estaba a la vista y lo que está a la vista no necesita y por eso tenemos esa propuesta donde se establece ese suelo tributario para que las deducciones no puedan llegar al infinito o lo que es igual a cero hay una propuesta

de la capitalización de las empresas hay otra de atención a las microempresas reduciendo sus costes fiscales directos e indirectos

de la explotación de patentes y otros resultados de las actuaciones de investigación y desarrollo incentivando el esfuerzo

hay una resolución de no deducibilidad de los gastos

a sociedades o de la no deducibilidad de gastos cuyo pago se realice incumpliendo la normativa sobre pagos en efectivo

euros está la limitación de los regímenes especiales está la propuesta de reformulación de regímenes especiales para las entidades dedicadas

para las sociedades patrimoniales para las agrupaciones de interés económico

de valores extranjeros hay otra sobre el mantenimiento de deducciones cuando hay inversiones en activos no corrientes nuevos en conservación

o en creación de empleo hay una más en relación a determinadas deducciones para reserva para inversiones productivas

y otra de limitación de los beneficios fiscales en fondo de comercio en compensación de bases negativas créditos fiscales y periodos transitorios

sobre sucesiones y donaciones tenemos dos resoluciones una sobre

las sucesiones entre familiares en línea recta estableciéndose un mínimo exento individual otra sobre el mantenimiento del régimen actual de las donaciones

descendientes o ascendientes en línea recta tenemos un octavo bloque

y en ella se plantea elevar el tipo general impositivo para las transmisiones patrimoniales

en el sector de la energía sobre los depósitos en las entidades de crédito sobre los premios a determinadas loterías y apuestas sobre el juego hidrocarburos gases fluorados y hay una propuesta también de resolución

algunas tasas que ya han sido experimentadas e implantadas en otras comunidades autónomas finalmente en el último bloque la ultima propuesta la última resolución se refiere

acuerda trasladar los criterios que aquí se establecen a las juntas generales tal como he comentado al principio de la intervención estas propuestas de resolución

generales la base de lo que se tramitará con la debida concreción en las juntas generales de los tres territorios y que hoy no se apure esa concreción tiene dos objetivos el primero respetar y facilitar el desarrollo del nivel competencial

el segundo propiciar un espacio flexible de encuentro con las demás fuerzas políticas que no suscriben este pacto pero que en la orientación señalada

en la misma dirección que hemos presentado el acuerdo del partido nacionalista vasco y el partido socialista hay espacio para la negociación para el encuentro para el saber sumar y por eso hoy se combina la determinación de obtener más recursos pagando todos y sobre todo los que están en mejor disposición para combinar como digo esa determinación con la prudencia de poder hacerlo comúnmente es nuestra intención que las propuestas de resolución

se voten en bloque o era nuestra intención en la medida en que pueda haber grupos que quieran apoyar alguna de las resoluciones como el señor maneiro ha explicado no hay ningún problema en que se saquen esas resoluciones para que se puedan votar separadamente hoy este parlamento

para que la fiscalidad empiece a formar parte de las políticas de igualdad para que los defraudadores lo tengan más difícil para que los ingenieros de la ilusión encuentren menos escapes para no tributar en las leyes para que

la voluntad del legislador como tantas veces se ha hecho hoy se da un paso un avance inédito en este parlamento para que los que ya pagaban

para atender las necesidades sociales y los servicios públicos la economía y el empleo de este país con más medios para demostrar sobre todo que cabe otra política que desde las instituciones se puede hacer una política alternativa

a la ciudadanía de atención a los más débiles y a los más desfavorecidos cabe otra política fiscal cabe otra política económica y social

a la que nos impone el partido popular en territorio común y a veces invadiendo competencias en territorio propio por lo tanto hoy en este parlamento sale una nueva disposición política en este país

pero que es ejemplo y voluntad política posibilidad política para el conjunto de españa hoy el partido popular tiene aquí un reto cabe una política alternativa una política que mira a los ciudadanos y una política que es infinitamente mejor para convivir y para poder hacerlo con un modelo de bienestar que está gravemente vapuleado atentado por el partido popular y por

rajoy señora garrido con respecto a la introducción de su resolución tendré que decirle que su noticia hoy aquí es

porque no tiene resoluciones porque no tiene política para euskadi porque no tiene propuestas ha estado intentando ocupar el tiempo en una reedición del debate de esta mañana por no tener no tiene ni ideas se ha pasado buena parte del tiempo cogiendo

gorospe de hace siete meses podría ser un poquito más original y tener ideas propias usted hoy nos ha hablado de que hay nuevos indicadores en la economía nos ha dicho

estamos en un momento en el que se empieza a dar la vuelta a la situación económica me imagino que se refiere

por el señor rajoy de que se va a mejorar en dos décimas

del crecimiento cuando hablan de que todo crece y de que se va a dar vuelta a esta situación yo me pregunto a cuál a qué situación si

a la pérdida de becas de los estudiantes de este país a que la justicia sea de pago

indecente al desmantelamiento de foronda a la reapertura de garoña a que en álava el diputado general

que se puede permitir el lujo de trasladar cuatro coma seis millónes de su bajada de impuestos a determinados colectivos de ciudadanos cuando es la diputación que menos recauda que peor situación económica tiene de las tres que no saca la cabeza y que además no tiene ni una sola idea y eso que tiene una oposición de lujo que todos los días le está diciendo

al diputado general porque no sabe lo que tiene que hacer pero efectivamente este es un problema

es un problema de dos tendrá que pensar también el partido nacionalista vasco si estamos en este acuerdo y en este rumbo de la política económica social y fiscal

y todo no cabe al mismo tiempo ni con los mismos conductores

avisos para navegantes para quienes no saben cuál es su rumbo guk

la señora garrido quisiera decirle que ya la señora quiroga marcó un poco cuál iba a ser

pero sobre todo lo que me ha preocupado es que ustedes crean

nos quieran hacer creer en el debate de hoy que el modelo fiscal vasco

el modelo fiscal no empieza con bildu aunque a usted parece que

y se ha hecho gracias al acuerdo de casi todos los grupos que estamos hoy aquí ustedes han pactado con nosotros nosotros con los socialistas etcétera

de todos los grupos que estamos en esta cámara

y aquellos grupos que más puedan acordar que tengan mayor capacidad de acuerdo serán los que vayan

adelante un modelo fiscal vasco que por cierto hablando de indicadores ha hecho que la comunidad

los mejores índices de competitividad pueda tener en el estado español luego creo que el camino que

nuestro partido compartiendo acuerdos con el resto de los grupos y partidos en fiscalidad y es el que hay que impulsar eta

unas buenas propuestas de resolución que consideran la fiscalidad como

como unas herramientas básicas para lograr una sociedad igualitaria solidaria y con mayor justicia social justicia social que ya desde los orígenes
del partido nacionalista vasco venimos reivindicando y trabajando eskerrik asko eskerrik asko etxeberria jauna erantzunen txandara pasaz

no necesito candil para poner que ustedes ponen la salvedad de las deducciones en gastos por lo tanto ese tan dicho suelo en el impuesto de sociedades no es tal cuando las empresas van a poder seguir

las empresas van a poder seguir llegando a pagar cero el impuesto de sociedades ustedes mismos lo ponen en la propuesta número diecisiete que no he necesitado candil para leerla lo mismo que no he necesitado candil para leerla no quería decírselo pero ya que usted me dice que necesito candil porque no sé leer

que hay una propuesta en la que ustedes confunden una reducción de base

y lo vuelven a hacer en su acuerdo se lo digo porque como usted sabe y conoce muy bien el impuesto del irpf sabrá distinguir qué es una reducción de base de qué es

al señor prieto en este caso que sigue en los mismos parámetros sobre política fiscal que han defendido los últimos años y teniendo en cuenta que entre nuestras propuestas de resolución muchas de ellas

entendemos que volveremos a recibir su apoyo respecto a las propuestas de resolución presentadas por partido nacionalista vasco y partido socialista y a pesar

trasladan al pleno el acuerdo que tienen firmado el acuerdo que han dicho una y otra vez que era lo que estaban trasladando aquí porque las propuestas que hoy han presentado aquí son tan genéricas que sirven para un fin y para el contrario

aquí al parlamento lo que ustedes han pactado si ustedes mismos lo dicen en su pacto ambos partidos se comprometen a la realización de un pleno monográfico de fiscalidad

modificación fiscal y yo me pregunto por qué no plantean aquí sus propuestas de modificación fiscal el pse ha estado presentando propuestas concretas en los anteriores monográficos de política fiscal en este parlamento por qué ahora no

están basadas en generalidades son una pista de aterrizaje para simples intereses partidistas el debate de hoy ha sido una escenificación para dar cobertura a un acuerdo basado en simples intereses partidistas desde euskal herria bildu ponemos sobre la mesa medidas fiscales concretas un modelo fiscal que está dando sus frutos

en la equidad y en la progresividad con mayúsculas y lo planteamos sin medias tintas lo planteamos sin pasos atrás avanzando siempre en un camino que en la realidad nos dice

andrea y muy breve señora presidenta para que no me riña luego la conclusión más evidente de este pleno de política fiscal

es que es evidente que hay dos modelos el modelo del partido nacionalista vasco y el partido socialista vasco que sube la presión fiscal a la inmensa mayoría de los ciudadanos vascos a los ciudadanos de a pie

que desgravan por la compra de una vivienda ese modelo que hace que paguen más los que ya pagan que sufran los efectos de esta reforma fiscal de la reforma fiscal del partido nacionalista vasco y el partido socialista los de siempre

que ustedes han acordado por las prisas por las urgencias haciendo hoy aquí una nueva escenificación y luego está el modelo del partido popular

creemos en este modelo es el que ya presentamos al conjunto de la sociedad vasca ya se lo presentamos a ustedes al partido nacionalista vasco al partido socialista ya iniciamos negociaciones con el partido nacionalista vasco es el modelo que baja la presión fiscal es el modelo que baja la presión fiscal a las familias es el modelo que sirve para reactivar nuestra economía

a aquellos sectores que más lo necesitan en este momento de crisis económica y es el modelo que va dirigido a aquellos sectores

de esta crisis y también en euskadi no sé si es el modelo de gipuzkoa

y creen en él el partido nacionalista vasco y el partido socialista vuelvo a repetir el partido popular tiene su modelo el que ya presentó a la sociedad vasca

en las juntas generales de álava a través de una proposición no de ley y ese va a ser el momento en el que ustedes se van a retratar si siguen apostando por su modelo

concretado que sigue en generalidades porque esto es una escenificación

por el que siguen apostando el de subir la presión fiscal a la inmensa mayoría de los ciudadanos vascos o se plantean una revisión de ese modelo y apuestan por la bajada de los impuestos como decía para reactivar la economía y para fomentar

que es lo que necesitamos en estos momentos y eso señorías va a ser el momento del acuerdo y el momento de la verdad y nosotros disposición total

por eso hemos presentado una propuesta concreta en las juntas generales de álava un proyecto de norma por la diputación foral de álava y sabiendo que no tenemos mayoría obviamente ese es el momento en donde ustedes veremos la aproximación que tienen a ese modelo

a la inmensa mayoría de los ciudadanos vascos como decía bi eredu

señora presidenta a la señora

le aclaro solamente hoy que hay un suelo que las deducciones tienen su limitación que lo verá usted

que se presentará para la fiscalidad en las juntas generales de gipuzkoa a no ser que quieran tomar la iniciativa les podemos pasar los textos

caben ambas formulas de iniciativa política

como en los demás territorios históricos en fin verá usted la concreción

hablando aquí en ese esquema que hemos hecho en esa hoja de ruta que hemos hecho el partido nacionalista vasco y el partido socialista de inaugurar de la política fiscal económica y social del país vasco con este pleno a partir de aquí con esas iniciativas en los territorios y ojalá

en el resto de políticas que se derivan de una mayor capacidad de recaudación de una mayor de recursos en relación a la señora garrido usted ha dicho que hay dos modelos de fiscalidad yo creo que hay tres

ha dicho que uno era el del partido nacionalista vasco y el partido socialista que ya sabe cuál es en este debate

los impuestos y yo diría que hay un tercero que es el de mentir y cuando se dice bajar subir que es el que hace rajoy yo creo que ese es un modelo además ampliamente experimentado luego lloriqueando y diciendo yo no quería claro yo no quería

pero efectivamente yo cuento hasta tres modelos el de la mentira el de engañar a la ciudadanía

y hacer otro el de esa coherencia que cacarean y que desde luego no tiene nada que ver la que cacarea el señor rajoy con la que práctica y con la que después se opone por ejemplo la señora aguirre en madrid en fin

han traído ustedes hoy aquí alguna propuesta de resolución con alguna propuesta de política fiscal para mejorar la situación económica y social del país vasco han traído alguna ninguna en álava están haciendo el ridículo

planteando a una diputación que está diezmada en los recursos por su ineficacia y su incapacidad política que además hay que bajar los impuestos y transferir rentas públicas a rentas privadas para

la de quién es decir ustedes con esa política pretenden tener más dinero para promocionar el empleo pretenden tener más empleo para la ley

pretenden tener más dinero para desarrollar las competencias y potenciar los servicios públicos dependen de la diputación foral de álava en fin es que son ustedes la incoherencia en marcha

son incorregibles es tremendo o sea

qué ambición de país qué miras más edificantes para la sociedad

cuando envían a la gente a la ciudadanía a la desesperación cuando se cargan las instalaciones que hay

encima nos dicen que quieren ser más pobres públicamente para redistribuir menos la riqueza mire no cabe eso no cabe no cabe una cosa y la contraria no cabe una visión social de los problemas que hay hoy y una visión antisocial como las que tienen ustedes por eso no caben las dos propuestas políticas

no cabe una iniciativa política para que haya más recursos y una iniciativa política para que haya menos una para atender a los ciudadanos y otras para dejarlos abandonados a su suerte
no cabe y lo que no cabe es mejor que no quepa eskerrik asko prieto jauna eta amaitzeko

bozkatu nahi duzu no finalmente no

primer bloque la uno las dos la seis la siete la ocho nueve diez

y veinticinco un segundo bloque tres cuatro cinco treinta treinta y uno y un tercer bloque